la verdad es que hemos discutido varias veces este tema en los últimos tiempos tres creo en este parlamento sin que el gobierno vasco haya dado ninguna luz ninguna solución que permitiera avanzar en la solución

anterior en cuanto a la descripción porque aunque nuestra iniciativa es anterior a la de upyd por mor del reglamento

en fin no va más allá de eso es muy preocupante este asunto

en una comparecencia solicitada por el grupo socialista

tanto la consejera de cultura como el viceconsejero han reiterado su intención de no pagar

a algunas asociaciones discriminándolas sin justificación

de su mismo sector por eso el objetivo de la iniciativa del grupo socialista es tratar de evitar los desmanes que están cometiendo la consejera y el viceconsejero de cultura

asociaciones y aumentárselas a otras de forma arbitraria es incomprensible que un gobernante no se avergüence ante la exposición pública de un sectarismo

maila honetako sektarismoaren erakusketa publikoaren aurrean voy entonces a dar un pequeño repaso

a las asociaciones afectadas la primera que aparece es la asociación de escritores de euskadi una asociación que utiliza cuyos socios utilizan o el castellano o el euskera

o cualquier otro idioma para escribir y es la única que

de nuestras dos lenguas oficiales sin discriminación de ningún tipo pues bien esta asociación que hace país que permite participar a escritores y defenderlos de cualquiera de nuestras lenguas oficiales se le retira la subvención en el proyecto de presupuestos y por lo tanto esa es la intención política de este gobierno que aunque lo retiró la mantiene

hace quince días deciden quitarle la subvención

a los sesenta y seis mil que cobra otra asociación de escritores legítimamente

pero que acoge asociados únicamente que escriban en euskera es una discriminación por motivos lingüísticos clara

no hay otra razón para hacer esto discriminación entre escritores vascos por motivos lingüísticos la cuestión es si

no son ciudadanos vascos no son responsabilidad del gobierno vasco no tiene el gobierno vasco la responsabilidad de fomentar la asociación de esos escritores para su defensa profesional para su

no olvidemos que son escritores vascos y por lo tanto periféricos dentro del estado

los andaluces los catalanes porque no están en el núcleo

estatales por lo tanto son escritores que necesitan que su gobierno les proteja pero además necesiten o no son escritores vascos y el gobierno no puede hacer dejación

de su responsabilidad y dejar abandonados unas partes de sus ciudadanos por motivos lingüísticos lo ha explicado muy bien la señora

la señora breñas en la comparecencia dijo

en euskadi dónde lo va a ser en una explicación perfecta de lo que supone

un escritor vasco que escriba en castellano no es cultura vasca la virtud de la barbaridad de lo expresado

del grupo eh bildu es que pone blanco sobre negro la trascendencia de lo que está haciendo el gobierno vasco estos escritores con esta asociación tengamos en cuenta que es una asociación en la que hay premios euskadi de literatura que hay

y que no hay ninguna otra que cubra como decía las dos lenguas oficiales y le quitan es que no hay por dónde cogerlo fíjense lo mismo hicieron hasta la legislatura pasada con los editores en castellano fue la legislatura pasada la primera vez

en castellano hasta la legislatura pasada solo se subvencionaba a los de euskera

con la lengua la asociación de productores vascos desaparece la partida nominativa que tiene asignada desde hace unos tres años y se incrementa en un treinta y tres por ciento la de otra asociación de productores del sector está bien que esté subvencionada pero por qué a una se la aumenta y a otro se lo quita

es que le quita la subvención con qué criterio una tiene unas treinta empresas asociadas

las dos son empresas de producción del audiovisual aquella coordinación que necesitan para poner en común la defensa que necesitan de su sector la hacen en el clúster de la audiovisual y resulta que el gobierno vasco la consejera el viceconsejero dice en esta sede parlamentaria que

una única interlocución en el sector es decir que deciden como si fuera el a quien premian y a quien castigan

de tener una única interlocución oiga es que el gobierno tiene la obligación de defender la pluralidad la obligación de defenderla no puede permitirse que un gobierno democrático anule la pluralidad y no son conscientes de ese principio democrático hasta el punto que lo utilizan como argumento claro no tienen ningún otro pero lo utilizan como argumento yo

al grupo nacionalista que apoya a este gobierno vasco qué ocurriría si por el mismo criterio

no subvencionar a los sindicatos únicamente al mayoritario porque

y tener una interlocución única todos veríamos que es una auténtica barbaridad que es antidemocrático que no tiene sentido nadie lo permitiría bueno y por qué se puede hacer eso con las asociaciones de productores

dos distintas tienen que unirse porque lo diga la administración es un ánimo intervencionista descarnado pero sobre todo responde a una visión ideológica de la sociedad cuando actúan así desde el gobierno que es una perspectiva nacionalista

de modular cuando están en el gobierno que es homogeneizar a la sociedad

inadmisible desde el punto de vista democrático es todo un sinsentido fíjese les voy a poner algún ejemplo para comparar lo que en los mismos presupuestos hacen

que están en la iniciativa pero como la federación vasca de libreros

específicas de librerías y les quitan la subvención pero fijémonos en otro caso

muy bien le conceden la subvención nominativa qué un instituto cultural francés es más importante es mejor para el tejido asociativo y productivo cultural vasco de euskadi que la asociación de productores vascos o que la

es más importante porque a esos que son suyos que pagan impuestos y que crean puestos de trabajo les quitan la subvención y a los otros que están en francia se la da

está bien pero no se la quite a los otros nosotros no se la queremos quitar a nadie que no se la hemos quitado a nadie cuando gobernábamos no se la quiten a los otros

dónde está el criterio de que tiene que haber una única representación y por qué tiene una subvención nominativa de treinta y cuatro mil euros superior

de escritores la asociación de trikitilaris que está muy bien

que promocionarla y hacer que pueda vivir esa asociación pero por qué esa tiene una nominativa y no una asociación de escritores vascos

desde un punto de vista político desde un punto de vista democrático y desde cualquier racionalidad

pero es que es la tercera vez en el parlamento aparte de las preguntas que les he hecho por escrito es que no tienen ustedes sensibilidad política vale

ninguna sensibilidad hacia sus administrados hacia la población vasca hacia aquellos que producen trabajan y arriesgan

en euskadi hacia un tejido cultural que es débil por razones de masa crítica que está tratando de sobrevivir con una gran dosis de voluntarismo

como el audiovisual como el artístico y ustedes deciden

bien hay otro tipo de exclusiones que son también durísimas por ejemplo la fundación blas de otero veintiocho mil euros

y solo quiero preguntarle al representante del partido nacionalista vasco que interviene hoy si hay algo más actual y más necesario que pedir la paz y la palabra si solo por eso no merecería la pena dar una subvención a la fundación blas de otero

contribuye tendrá la dignidad de salirse aunque es bastante indigno que se salga

obvias bien y resulta que además como les he explicado otras veces

todas esas partidas nominativas están en los presupuestos

están ahí y se niegan no quieren de manera incomprensible y tampoco son cantidades importantes fíjense las cinco asociaciones que yo he citado en mi iniciativa el monto total de la subvención para las cinco son unos ciento cuarenta y dos mil euros unos veinticinco mil euros de media

he citado como contrapunto la otra de productores la francesa

ya está bien creo para terminar ahora que no tienen política cultural

meses pero sí actúan con sectarismo y no han hecho nada aún salvo quitar subvenciones de forma injustificada y lo que más

es que un consejero una consejera un viceconsejero puede equivocarse puede empecinarse pero no entiendo que un gobierno con un lehendakari al frente no sea capaz de corregir

que hoy el partido nacionalista vasco reconsidere su postura plasmada en una enmienda que luego comentaré y apoye que no se retire la subvención ni a estas asociaciones

sustatzea da y no lo consideramos un problema como se intentó

pero de diferente manera porque no están en la misma situación ez baita justua biak berdin tratatzea

eso sí que es talibanismo y laxismo lingüístico y xenofobia cultural

gracias señora presidenta con su permiso desde el escaño porque voy a ser muy breve

voy a decir que hemos firmado la enmienda de transacción con

compartimos los criterios y las explicaciones expresadas por ellos en

reiterativo y repetitivo sí que nosotros hemos aportado un tercer punto en relación con ponerle algunos deberes

a comprobar cómo se gestiona la prórroga en materia de subvenciones culturales porque es muy importante se está demostrando cada día más que se demuestra la necesidad de aclarar

a la prórroga presupuestaria y queremos hacerlo concretamente en esta materia cultural

hemos pedido que se presente la primera quincena de septiembre un informe que concrete y detalle la política de subvenciones que llevará a cabo

por el primer punto de la proposición no de ley de la enmienda de transacción la verdad que estamos en un momento de indefinición en estas cuestiones no hay presupuestos política económica que la sustente hay que cumplir una prórroga cómo se va hacer esa cuestión eso es algo que nos preocupa y eso es algo que queremos comprobar y que queremos supervisar

que en estos temas que debieran ser más de todos y

el gobierno y el partido nacionalista vasco se vean cogidos absolutamente cogidos y prisioneros de las exigencias de eh bildu

subvención nominativa sobre su aplicabilidad sobre los argumentos del departamento respecto de los

pero e aquí que se nos ha planteado por los partidos nacionalistas españoles un debate ideológico de modo

de esa parte de la cultura vasca minorizada

lo consideran un ataque a su posición ideológica por lo que se sienten obligados a tomar decisiones que mantengan

cumplen o no con los requisitos establecidos y mucho menos

dejando claro que esa parte de la cultura vasca minorizada no la consideran como propia al contrario de lo que décimos nosotros que

en euskera castellano o incluso en otro idioma es la nuestra es un debate planteado además

que ante la gran cantidad de argumentos aportados por la consejera y el viceconsejero no se oponga ningún argumento que demuestre la supuesta posición equivocada del departamento sino que dichos argumentos se condensen en una retahíla de insultos y barbaridades dirigidas tanto a la consejera como al viceconsejero insultos y barbaridades tales como llamarles sectarios

impresentables indefendibles incomprensibles que atacan a la pluralidad social discriminatorios etcétera mintiendo

no va a subvencionar a esas asociaciones como que

las subvenciones nominativas fuesen la única fórmula de subvención les han repetido por activa y pasiva que van a recibir las subvenciones lo que pasa que no va a ser de un modo nominativo ante esta situación entenderán por qué digo que los partidos nacionalistas españoles han planteado un supuesto debate ideológico y lo han hecho desde las tripas quiero dejar claro

lo que les criticó es que sean nacionalistas excluyentes y sectarios

incluyentes y progresistas que somos hemos aportado

sí y además respetuosos

alejadas de todo planteamiento ideológico excluyente y para ello remito a todos los interesados también a usted señor pastor a los diarios de sesiones y comisiones de este parlamento referidos a este asunto pues esto como ya se ha dicho no es más que otro acto de una escenificación

deslegitimación del gobierno y la imposición de un determinado modelo nuestra posición queda clara en el texto de la transacción que hemos alcanzado con euskal herria bildu y como pueden ver no puede ser más incluyente y menos discriminatoria puesto que apuesta por el fomento de toda la cultura vasca

y plantea una política de subvenciones culturales aquí voy a leer la propuesta el primer punto de upyd una propuesta de subvenciones decía alejada de sectarismos arbitrariedades o discriminaciones

fomentar y proteger el asociacionismo en el campo cultura y a tener siempre presente

bien se desarrolle en euskera o en castellano nuestras dos lenguas oficiales o incluso en alguna otra diría yo como ven todo esto que acabo de decir

en nuestra enmienda de transacción que como ven es absolutamente incluyente también es la misma posición que defiende ha defendido y ha explicado profusamente el departamento pero para debatir señores nacionalistas españoles hay que querer y no utilizar el insulto como argumento

muchas gracias presidenta cree el ladrón que todos son de su condición y suelen creer habitualmente los nacionalistas vascos que quienes no somos nacionalistas somos nacionalistas españoles en absoluto en absoluto somos nacionalistas españoles somos ciudadanos eso sí somos ciudadanos y en fin y hablar de nacionalismo

y a los hechos me remito y este es uno de estos hechos efectivamente cultural sectaria de este gobierno porque el nacionalismo es sectarismo y el nacionalismo vasco es sectarismo sin ningún tipo de dudas dichas dulcemente

lo cierto es que lo que ustedes han venido aquí a plantear son excusas baratas para sustentar el esperpento y el disparate es decir el esperpento nacionalista y el disparate nacionalista de toda la vida aquí

en relación a la política cultural de este gobierno es discriminación abusos

a veces por motivos lingüísticos otras veces discriminaciones por motivos ideológicos y siempre discriminaciones por motivos sectarios por eso ustedes deciden apoyar determinadas asociaciones

castigar a otras defienden como siempre han hecho

premian a los de su cuerda y tratan de laminar a los que piensan de otro modo o a los que no utilizan el euskera o a los que no piensan como ustedes esto es el

y lo estamos comprobando en política cultural es obvio que para este gobierno

de segunda categoría nosotros no tenemos ningún problema en que diferentes asociaciones puedan seguir recibiendo subvenciones en absoluto no hemos criticado esto

en determinadas partidas o que determinadas asociaciones han incrementados los dineros públicos recibidos no hemos criticado esto en absoluto lo que hemos criticado es que mientras ha ocurrido esto la consejera nos ha dicho que por razones económicas por razones presupuestarias se retira la subvención a determinadas asociaciones y a esas asociaciones que están enumeradas en esa enmienda transaccional por lo tanto deciden premiar como siempre han hecho a sus amigos a los de a los que piensan como ustedes y deciden castigar al resto la historia de siempre del nacionalismo priorizar a los de su cuerda y marginar

ciudadano vasco es decir el patrón de buen nacionalista que para ustedes es básicamente lo mismo con

es la historia de siempre del nacionalismo de todos los nacionalismos sectarismo dirigismo y arbitrariedad y aquí llevamos sufriéndolo demasiados años por todo esto le apoya eh bildu claro quién le apoya a usted

eh bildu los más talibanes del lugar se unen a ustedes para defender una política talibanesca esta es la realidad de los

que no hay que tratar a todos por igual efectivamente premian a los de su cuerda premian a sus amigos y deciden laminar a los que no piensan como ustedes

no hay que tratar a todos por igual y aquí estamos hablando de cultura no estamos hablando que yo sepa de política lingüística hay que apoyar la cultura se haga en castellano se haga en euskera no se haga en ningún idioma una asociación o en otra efectivamente la cultura se puede hacer

aquellas asociaciones que crean cultura y la cultura no la crean solo sus asociaciones las que ustedes consideran que son sus asociaciones

a los contenidos culturales y a las propuestas culturales asociaciones no hay que priorizar absolutamente nada hay que observar el contenido cultural no el lingüístico o el ideológico como ha venido ocurriendo

otra vez aquí en fin solo me queda dar las gracias al partido popular y al partido socialista de euskadi por la firma de esta transaccional e insistir

es una contradicción en los términos gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

bueno señor arieta araunabeña la verdad es que

no escuchaba una defensa tan floja tan débil en este parlamento

le conozco si además de su impulso de su vigor en la exposición de que utiliza argumentos cuando los tiene y que no haya utilizado argumentos

a lo que ha dicho el departamento que ahora le voy a contar yo lo que ha dicho el departamento indica

pues bueno el tono está bien pero ha hecho una defensa de estas

fíjese se ha quejado de que haya dicho que

sean sino que el comportamiento de este gobierno las decisiones que toma y lo mantengo es sectario arbitrario discrimina a los ciudadanos vascos es verdad es verdad y yo he dado datos y he comparado con asociaciones usted ni uno igual espera la réplica para dar alguno espero que no y no espero de usted esa cobardía política porque yo no podré rebatirlo

no ha dado ninguno mire habla de discriminación positiva tanto usted como la señora breñas de eh bildu habla de discriminación positiva en el sentido por ejemplo lingüístico de el euskera

y la aplicamos todos fíjese hasta el punto de que la legislatura pasada se mantenía la nominativa escritores euskaldunes en sesenta y seis mil euros y la de escritores

eso es el dato del presupuesto y eso es lo ejecutado y ustedes lo que quieren es quitar a los que escriben acogen a escritores en las dos lenguas no utilicen argumentos

dónde está ahí la falta de discriminación positiva si ese es el argumento

sesenta y seis mil cero euros dónde está la discriminación positiva

ustedes dos pnv y bildu dicen que es que deben de presentarse se les ha dicho que deben presentarse a otras convocatorias

es que no hay y yo sí creo que usted mienta porque usted sí sabe que no hay

no hay hay una para festivales que es para festivales y actos parecidos y nada más no se puede presentar una asociación para su actividad regular de promoción de su sector a una convocatoria de cultura porque no hay

no hay por eso la subvención directa yo en fin argumento como me parece señor egibar como usted

la subvención directa es la única fórmula y además la más transparente ahí está esta asociación por estos motivos tanto el departamento sí ha dado razones ha dicho que algunas de ellas por ejemplo la blas de otero la asociación de productores vascos no tenían suficiente actividad o

usted sabe que los técnicos de la administración para dar una subvención

de las cosas que va a hacer de las actividades que va a tener

tiene que presentar las facturas y eso pasa por intervención y que han pasado todas esas asociaciones todas y no ha habido ningún problema

la consejera en la comisión cuando dice y ustedes han cogido el argumento con mucha vehemencia que son por ejemplo la asociación de escritores solo en castellano que es mentira

en la que concurren son en cualquier lengua y por supuesto acoge escritores en castellano y en euskera en nuestras dos lenguas oficiales si no tienen argumentos no utilicen torticeros

y respecto a la transacción yo solo les diré que

dice que el departamento viene a decir siga actuando respeto a las subvenciones como las ha hecho hasta ahora estamos en completo desacuerdo porque ya le digo que es una actuación sectaria discriminatoria que no trata

y respecto al apartado de bildu que es el segundo punto

habla únicamente de una de las asociaciones en cuestión de la de productores vascos con lo cual se comporta como el gobierno

en la misma senda claro con el mismo sustrato pero dice claramente que

por qué las demás no por qué no qué le han hecho la federación de librerías que están trabajando intensamente

qué les han hecho o los escritores o cualquier

pero es que encima y yo le advierto lealmente señora breñas dice

que el departamento revise la posibilidad

no adquieren ningún compromiso de dar esa subvención y entonces únicamente a usted le da igual

o no se ha enterado y no se lo van a dar porque es que usted estaba comiendo la comisión hace quince días cuando la consejera dijo que no les iba a dar subvención a la asociación de productores vascos y usted dice que bueno que lo revisen y si no

las dos intervenciones del señor maneiro y del señor reyes han vuelto a ser desde las tripas por lo tanto argumentos ninguno pero yo voy a intentar

en primer lugar ustedes en ningún momento han justificado por qué estas subvenciones tienen que ser nominativas aunque no cumplan los requisitos por lo tanto como todo dimana de ahí todo lo demás queda en nada en segundo lugar dice que es mentira que hay subvenciones el que miente es usted porque ya en el departamento por ejemplo le dijo y le voy a poner el ejemplo claro

cómo iban a recibir desde patrimonio por lo tanto no mienta porque además está en los diarios de sesiones por lo tanto el que miente es usted señor reyes así de claro qué quiere que le diga y además les invito a todos para que lo miren

hombre dicen ustedes el señor maneiro

que todos los nacionalismos son sectarios y que

es un contrasentido y dice que bueno que ustedes no son nacionalistas hombre para no ser nacionalistas señor maneiro tienen ustedes y además así le denominan

un montón de sistemas nacionales de agencias nacionales institutos nacionales etcétera etcétera etcétera

y en esto el lenguaje no es neutro señores puesto que ustedes

con el ámbito estatal saltándose incluso lo que dice la propia constitución aunque sea de un modo eufemístico sobre las nacionalidades porque no habla de naciones habla de nacionalidades pero le voy a leer la definición de nacionalidad de

por lo tanto si hay aquí alguien que son nacionalistas son ustedes pero ya les digo que todo el ámbito estatal es nacional para ustedes pero ese además es un

porque quita a todos los demás ya sé que usted está encantado con eso pero no me diga que no es nacionalista usted es el prototipo de nacionalismo excluyente y retrógrado

pero mire además pero fuera de eso de lo que les acabo de decir ustedes cuando hablan dicen no hay que modificar el actual estatus

en que lo importante es salir de la crisis como si no fuese precisamente una gran dificultad añadida para salir de la crisis el modelo social y económico español

español eso también es nacionalismo nacionalismo mediante la legislación básica se hace y desde esa fuente competencial sin límite que han decidido que sea el artículo ciento cuarenta y nueve punto uno de la constitución un modelo español por cierto

sí señores ustedes los nacionalistas españoles están haciendo eso sin embargo

para que estemos en mejor situación que en españa y lo hacen porque su objetivo es el modelo centralista y excluyente que ahora por ejemplo el partido socialista lo está formulando

ahora lo llama modelo feudal y que usted señor maneiro ya rápidamente

es el que ustedes defienden que es el que defiende upyd usted lo ha dicho así

por qué quieren cargarse el modelo institucional para que encaje mejor

vamos quitando y todo y lo de hoy no es otra muestra más que ese proceso de ese modelo señores no hay más que eso del mismo modo podríamos continuar cuando utilizan la persecución del fraude fiscal para cambiar el cambio de modelo etcétera cuando sabemos que las competencias para los grandes defraudadores

qué es lo que han hecho ustedes dicen que no hay que cambiar ese modelo y ese sistema

la política social de vivienda con empresas situadas tenían la sede en un paraíso fiscal mire yo para finalizar le quiero decir que nosotros no discriminamos a nadie sabemos que todos los vascos tenemos los mismos derechos más allá de las ideologías

y menos mediante la imposición nosotros cuando estamos hablando

la cultura minorizada estamos hablando para todos no estamos diciendo que renegamos de la otra cultura que no sea

en otro idioma para nada para nada renunciamos y estamos diciendo nosotros estamos viviendo y queremos ser incluyentes el problema que tienen ustedes es esa reacción que tienen que les he dicho desde ese nacionalismo vasco absolutamente excluyente

no tengan miedo a reconocer lo que son porque les irá mucho mejor

y además la sociedad vasca se lo agradecerá porque así no hay caretas muchas gracias eskerrik asko

tenemos la enmienda transaccional firmada entre eh bildu y el grupo socialista no sé si finalmente han firmado otra enmienda transaccional el grupo nacionalistas vascos con el grupo popular parece ser que sí

transaccional para que pudiera ser firmada también por un servidor de parte del grupo popular y del grupo nacionalistas vascos nosotros hemos decidido no firmarla y vamos a defender nuestra enmienda de totalidad

una enmienda con el grupo que apoya al gobierno en este asunto y más teniendo en cuenta que nuestra enmienda

la exigencia a este gobierno de que no haya ningún tipo de recorte en la sanidad cosa que tampoco se ha pretendido incluir en esa enmienda transaccional entre el grupo nacionalistas vasco y el grupo popular que por lo demás tampoco dice nada

ni pone tareas al gobierno yo creo que los grupos especialmente los grupos de la oposición no estamos aquí

al gobierno seis meses después sino más bien para plantear

la transaccional que ustedes han firmado pero ya digo que tampoco dice demasiado

está la enmienda firmada entre el grupo socialista y el grupo eh bildu

pero que en todo caso por razones conocidas tampoco iba a firmarla en conclusión me queda por defender la enmienda de totalidad que en nuestra opinión es la mejor enmienda

por ir al origen de la iniciativa presentada por eh bildu

y protestas en el interior de los hospitales porque sin duda

más vulnerables a los enfermos y al resto de usuarios de la sanidad pública por lo tanto nosotros estamos en contra

acampadas o protestas en el interior de los hospitales en otros lugares y en fechas similares los trabajadores del sector realizaron protestas en el exterior de los hospitales

razonable una cosa es llamar la atención sensibilizar a la población y a los usuarios protestar presionar a la administración y otra cosa bien distinta es

el aval ni el visto bueno de upyd entrando ya en lo que es la moción desde upyd volvemos a proponer lo que llevamos reclamando en los últimos años que se mantenga una salud pública de calidad universal y sin recortes los recortes por mucho que se empeñe el señor darpón

que se empeñe el gobierno vasco no son solo cosa de madrid no son solo cosa de los españoles

llegado a euskadi los recortes también han llegado a la sanidad vasca y nosotros estamos en contra de esos recortes que también aquí se están aplicando

disminuyendo de forma notable los fondos para investigación y las ayudas a las asociaciones o paralizando inversiones necesarias por lo tanto aquí sí

vascos ni el grupo popular han querido incluir la exigencia que planteaba upyd de exigir efectivamente el gobierno que no impulse nuevos recortes

de momento a estos no han llegado los recortes ni a los altos cargos

a los complementos que por cierto fue una de las exigencias que nosotros planteábamos también en aquella ya lejana negociación presupuestaria que se corrigiesen

siguen cobrando tampoco han llegado los recortes a eso todavía seis meses después

cada vez más integral con mayores y mejores coberturas y que se acabe o disminuya de forma notable

y eso desde luego no se consigue con recortes presupuestarios y con reducciones de personal al contrario también en épocas de crisis tenemos que dotar a los servicios públicos básicos y la sanidad lo es de lo necesario para cumplir dignamente con calidad su función

hay otros sitios donde recortar y así poder obtener los recursos que la sanidad necesita

en euskadi que habría que hacer para poder tener recursos públicos no voy a hablar otra vez

y tantas otras reformas que quedan pendientes seis meses después del cambio de gobierno

colectiva que haga todos los esfuerzos necesarios para acordar con los representantes sindicales unas condiciones laborales dignas el consejero decía la semana pasada que la negociación colectiva estaba y está abierta que para osakidetza es una prioridad y que nos encantaría decía tener un acuerdo

laborales esperamos que efectivamente esto siga avanzando porque de momento el asunto está parado en todo caso lo que de verdad importa

un servicio de calidad y humano eso solo se consigue si los trabajadores de la sanidad pública se sienten

y a día de hoy no se sienten bien tratados sino todo lo contrario se deben sentir bien tratados bien valorados y se deben dar cuenta que efectivamente se les tiene en cuenta precisamente lo que está fallando últimamente en fin esta es por lo tanto nuestra enmienda de totalidad que nosotros hemos presentado y que finalmente

antes de empezar con el texto voy a abordar un poco el contexto hoy se están organizando los trabajadores en osakidetza de hecho ya lo han hecho en los grandes hospitales

presentando al parlamento miles de firmas de trabajadores y usuarios con manifestaciones en el propio hospital y contra la política del gobierno

basurto con manifestaciones de los representantes de los trabajadores contra la política de personal acampadas se ha mencionado aquí previamente txagorritxu con manifestación de trabajadores y encierro parcial de miembros pertenecientes

y parados que agrupa a trabajadores

y que ya han pedido amparo al parlamento y comparecer en comisión de salud señorías este es el contexto y esto a qué le suena

indica la existencia de un fracaso en la política de persona cómo hemos llegado a esto

la comisión efectivamente ha convocado varias reuniones de mesa sectorial para teóricamente negociar las condiciones laborales para el dos mil trece y quizás siguientes pero se presentó con un producto cerrado esto es loque hay incremento de jornada eliminación de días de libre disposición de nuevo más incremento de jornada

y tiene ya tomada su postura hagan ustedes un esfuerzo es todo lo que ofreció

y cómo explica esto el consejero pues dice no estamos maduros para un acuerdo

y como consecuencia el decreto trescientos cincuenta y uno barra dos mil trece de veintiuno de mayo es decir decretazo y ahora vamos con el texto esta moción consecuencia de interpelación trae su consecuencia

que ya hemos mencionado que realizó la representación del personal en basurto pero como ya hemos comentado no es única no es solitaria sino que está

contra el modo de funcionar impositivo por otro lado

parece que tienen un aspecto semejante sin embargo detrás hay una gran diferencia como se ha dicho antes firmar en este momento con el gobierno vasco parecería dar un aval a su política de personal y no estamos de acuerdo porque el grupo socialista en su enmienda

a la negociación con los trabajadores naturalmente a explicar sus líneas rojas pero también a no cerrarse a posibles y diferentes ofertas a la única presentada por ellos

demandada por determinados y diferentes colectivos y que supone una fórmula de mantenimiento del empleo y quizás incremento del empleo sin incrementar el gasto

redistribuyendo los modelos de contratación especiales llamados auto concertación

guardias localizadas que significan horas extraordinarias

todas estas fórmulas pueden sustituirse por jornadas ordinarias eso significaría un incremento del empleo pero se han cerrado a negociar nada han presentado una fórmula de incremento de jornada anual y punto pero con el desempleo y un paro galopante que están asolando a la sociedad

que detrás de ella solo hay horas extraordinarias así pues lo que le instamos al gobierno

a convocar la mesa sectorial a la búsqueda de acuerdos a la discusión de todas las posibilidades y no solo a sus apriorismos

teniendo en cuenta que lo más grave de su fórmula termina recayendo sobre el grupo más vulnerable es decir los trabajadores temporales hoy ya en el paro estamos hablando de un colectivo

el resto de los puntos de todas las iniciativas evidentemente van a la defensa del sistema sanitario público vasco y de calidad

y le pedimos que lo sostenga económicamente que no haya recortes que agravarían además la situación de la población en peor situación ya perjudicada por el empleo precario sin derechos o directamente en paro así pues nuestra posición es contraria a un acuerdo que sobre el papel parece inocente

que nosotros ni compartimos ni apoyamos y sí hemos firmado con el grupo con el que sí coincidimos

falta de diálogo y negociación y sentimos mucho que por razones ajenas a lo que es la política social y en este caso la sanitaria el grupo upyd no apoye esta enmienda porque creemos que su discurso

podría asimilar perfectamente por los dos grupos firmantes de esta enmienda

decía que bueno parece que los textos acordados

el partido nacionalista vasco y el partido popular no tienen muchas diferencias en principio son escasas las diferencias pero lo que ha aprovechado aquí

este tema bueno no sobre este tema para traer aquí su discurso porque los discursos planteados aquí no tienen nada que ver con lo que estábamos debatiendo

que ha traído aquí bildu que no tiene nada que ver como decía con la interpelación que fue sobre los incidentes acaecidos en el hospital de basurto

cuestión sobre la que todos los grupos en principio en esta cámara tendríamos

obviamente las diferencias están ahí y por eso se han llegado a acuerdos entre los grupos que

yo creo que no podría presentar objeciones salvo que se justifiquen las objeciones en esos discursos a los que hacía

discurso absolutamente demagógico sobre el empleo público y sobre la contratación pública en osakidetza por parte de algún grupo que ha tenido responsabilidades de gobierno

y por parte de un grupo que acató sin rechistar la orden

un cinco por ciento por lo tanto señora roncal está claro que cuando el partido socialista gobierna hace unas cosas y cuando el partido socialista está en la oposición hace

y se dedica a hacer pura demagogia me voy a centrar en la enmienda de transacción suscrita porque señala lo siguiente insta al gobierno vasco a garantizar y reforzar el sistema vasco de salud que debería seguir siendo público

de euskadi en principio no veo por qué alguien no puede estar de acuerdo con este párrafo y el segundo insta al gobierno vasco a impulsar y convocar

así mismo como vía de interlocución y colaboración con los trabajadores y sus representantes sindicales para en su caso adoptar medidas al objeto de mantener y mejorar la estructura

al objeto de la moción que hoy debatimos y el tercer párrafo señala que se siga dotando a osakidetza de los recursos humanos y medios económicos necesarios para garantizar a todas las personas

ofreciendo una cobertura pública universal tanto en el acceso como en sus prestaciones y tomando como eje central a las personas

en este último párrafo se ha introducido una cuestión también que a nosotros nos parecía esencial que es el tema de la sostenibilidad de la sanidad y la gestión eficiente de los recursos las prestaciones sanitarias para nosotros y ya lo repetimos en otro debate que tuvimos ocasión de tener

es importante garantizar esa sostenibilidad del sistema nacional de salud

porque para nosotros seguir avanzando en el estado de bienestar es adoptar medidas que garanticen la estabilidad manteniendo la protección de la salud a los ciudadanos y blindar la sanidad pública de los efectos de la crisis económica es que siga siendo pilar del estado de bienestar porque al final todos somos conscientes de que es el servicio público más valorado entre los ciudadanos en definitiva

de la que viene que ustedes en definitiva con su defensa hace dos semanas justificaban esa acampada que tuvo lugar en hospital de basurto y las protestas ahí realizadas cuando nosotros a través del texto que hemos

suscrito con el partido nacionalista vasco lo que reivindicamos es que las conversaciones los acuerdos

establecidos y en este caso hay una mesa sectorial que se convoca que tendrá que convocarse que tendrá que impulsarse para que los acuerdos lleguen en su caso en ese ámbito en el seno de esa mesa sectorial pero desde luego no vamos a justificar actuaciones como las que vimos

por los de siempre en el hall del hospital de basurto por lo tanto nosotros

y es el que vamos a apoyar y sí que lamento que algunos aprovechen

iniciativa concreta que era para un aspecto muy concreto para hacer su propio discurso el discurso de siempre y algunos además
quedan en evidencia porque desde luego no tiene nada que ver con el discurso que mantenían en la legislatura anterior nada más eskerrik asko

a la hora de plantear nuestra propuesta sobre esta moción

hemos querido instar a los responsables del departamento de salud a que mantengan y fortalezcan el sistema vasco de salud siempre respetando los principios de solidaridad

y participación de las personas destinatarias de sus servicios nuestro grupo apuesta por un sistema sanitario vasco que sea público universal y de calidad además de sostenible por lo que instamos también a que se gestione los recursos disponibles de la forma más eficientemente posible

es precisamente asegurar que todas las personas residentes en esta comunidad autónoma tengan garantizada la asistencia sanitaria por eso exigimos que cobertura sanitaria sea pública y universal tanto en el acceso como en sus prestaciones

por otro lado compartimos la necesidad de adecuar la estructura organizativa y asistencial de nuestro sistema sanitario también imprescindible para garantizar su sostenibilidad y para poder seguir mejorando

así mismo creemos necesario recuperar el diálogo y el consenso en lo relativo a las condiciones laborales estamos en un momento muy complicado hay una gran disminución de recursos económicos a causa de la coyuntura económica que estamos padeciendo vivimos momentos de gran confrontación laboral

a través de los medios de los que nos hemos dotado por eso instamos

los máximos responsables del departamento ya han mostrado su voluntad para el diálogo y el acuerdo

las puertas para la negociación siguen abiertas el consejero lo ha asegurado

el gasto sanitario se va a mantener respecto a ejercicios anteriores a pesar de todas las dificultades beraz ideia nagusi horietan oinarrituta

gracias señora presidenta nos llevamos las manos a la cabeza

pero estas no han sido protestas violentas y creo que hasta los jueces dicen que aquellas protestas que no son violentas

así que no menospreciemos los recursos los escasos recursos que tienen los trabajadores frente al poder de osakidetza es que no tiene otra posibilidad de recurso para plantear su oposición

señora garrido qué quiere que le diga léase el diario de sesiones que se le ha explicado un montón de veces

un tema que es legislación básica es de obligado cumplimiento mientras que legislación complementaria no es de obligado cumplimiento

que no entiendo cómo ha podido firmar el punto número cuatro con el pnv o si el pnv cree que el pp va a apoyar ese punto porque habría que preguntarle cómo lo va a hacer con el copago

con otros copagos que ya ha decidido el señor rajoy que hay que poner práctica lo va a hacer como cospedal como

yo que el pnv desde luego no me creería este apoyo del pp

al pnv que desde luego la actitud que ha presentado efectivamente es esa las palabras son muy bonitas pero como siempre perdón la música es bonita pero le faltan los hechos y los hechos no se corresponden con las palabras usted aquí ha planteado una imagen amable de diálogo y de negociación

efectivamente nadie esa es la actitud pero claro luego los hechos no tienen nada que ver no hay diálogo no hay negociación

esfuerzos por supuesto que por lo visto el consejero se reunió y así nos lo señaló en varias ocasiones con los sindicatos pero oiga eso no es negociar

pero de ahí no sale una conclusión positiva para los trabajadores así que

y menos declaraciones y más hechos más ir a la mesa de negociación convocarla e ir con un espíritu más abierto y no con un tema cerrado esto es lo que hay

que va a ser temporal y cuando mejoren las cosas ya hablaremos así que nada más que volver a reiterarle al señor maneiro que tenga en cuenta que la política social

en este momento su voto sería muy importante para defender a los trabajadores

señor ubera no patrimonialicen tanto la defensa de los derechos de los

desde luego defender a los trabajadores no es secundar o promover acampadas que parece que últimamente les gusta mucho porque además

poco respeto a los trabajadores que están haciendo su trabajo en el propio hospital en este caso como están haciendo los propios trabajadores

y también evidencia poco respeto a los pacientes que acuden a ese hospital obstaculizando su entrada y desde luego

no viendo las cosas como habitualmente se ven en un hospital o utilizando

que hamaiketako de turno por lo tanto eso no es defender a los trabajadores defender a los trabajadores es

desde luego el acuerdo que hemos suscrito con el partido nacionalista vasco a que el gobierno se ponga las pilas y convoque los órganos

impulse los cauces legalmente establecidos que para eso tenemos la mesa sectorial

con la interpelación que presentaron y con esta moción y con el debate que han hecho se retratan nuevamente por lo tanto estamos en las antípodas como no podía ser de otra forma y señora

porque usted y yo hemos compartido la pasada legislatura muchas horas cerrando acuerdos y usted tratándome de explicar que el gobierno vasco y que el departamento de sanidad y el consejero de turno no tenía más remedio que hacer algunas cuestiones y poner en marcha algunas actuaciones como las que puso

la reordenación sanitaria los fines de semana cómo desapareció la atención sanitaria

a la mañana cómo se cerraron los centros de salud recordar también cómo había problemas con las sustituciones del personal y tengo que recordar muchas cosas que usted me trataba de explicar por qué la coyuntura económica era la que era

a este gobierno porque también sabe que somos muy críticos con las actuaciones de ese gobierno

hay que tener un poquito de coherencia y sobre todo cuando uno hace unos meses ostentaba responsabilidades

patxi ex lehendakari mejor dicho patxi lópez hoy aquí presente acataba muchas decisiones sin rechistar absolutamente yo no le vi

ni a ningún miembro de su gobierno ni a ningún miembro de la bancada socialista que entonces se sentaba aquí a la izquierda defender con ahínco

cuando se rebajó el sueldo el cinco por ciento a los funcionarios eso solo lo hizo el partido socialista y eso lo hizo igual que congeló las pensiones porque a diferencia del partido popular el partido popular no ha congelado las pensiones el que aquí ha congelado las pensiones y ha rebajado el sueldo a los funcionarios ha sido el gobierno del partido

señora roncal que ya nos conocemos aquí cada uno tiene su trayectoria me parece muy bien que ahora quieran marcar ese perfil de izquierdas ese

pero cada uno tiene lo que tiene y por eso precisamente ahora pues están en la oposición en el gobierno de españa por eso esperemos hasta que también sigan en la oposición del gobierno de españa

psoeko ordezkariak esan duenean que lo que les unía era precisamente

estar en contra de la falta de diálogo y de la imposición realmente es llamativo

de decisiones basándose en este tipo de criterio ya lo han comentado anteriormente aquí que la reducción de cinco por ciento en el salario y es que incluso en el año dos mil nueve a bombo y platillo anunciaron

y que acto seguido no se cumplió o sea en el año dos mil diez ya se dejó de cumplir entonces de una forma unilateral se tomó una serie de decisiones que no eran para nada favorables a los intereses de los trabajadores eta azkenik guk esan berriro